presentziako modeloetan eta herritarren arretan también cabe destacar la puesta en marcha de experiencias de trabajo colaborativo a través de las redes colaborativas las comunidades de prácticas y los equipos de innovación los resultados alcanzados en la línea estratégica

los que han tenido una mayor repercusión externa con proyectos tan significativos como irekia y open data euskadi el vigente plan de innovación pública finaliza a la conclusión del presente año y sabemos que el gobierno se ha comprometido a elaborar un nuevo plan

dos mil dieciséis ante este compromiso nos interesa saber señor erkoreka cuáles son las orientaciones principales para la elaboración del plan de innovación pública dos mil catorce dos mil dieciséis besterik ez

por la que usted entiende que determinadas manifestaciones en un proceso judicial por persona imputada ante algo en lo que ni yo como lehendakari ni el gobierno tienen nada que ver y que tales manifestaciones tienen en su justificación su consideración de graves acusaciones que ponen en cuestión al lehendakari

si esa motivación estuviera basada en una credibilidad como ofrecen las formuladas por la misma persona imputada en relación a que participó conmigo según lo que él dijo conmigo en un encuentro largo y tendido en la playa de la arena tal y como dijo en el proceso judicial

nunca he mantenido ningún encuentro en la playa de la arena ni largo ni tampoco por supuesto tendido

con un proyecto importante para bizkaia y euskadi y que tenía su desarrollo

que como cualquier agente representativo pudiera hacer me interesé como responsable del partido nacionalista vasco es cierto mi actuación ante esta empresa de la misma forma

obré con absoluta honestidad tratando de conocer los proyectos de esa empresa que incluso y eso no se dice visité y lo reconozco visité

las declaraciones que usted cita están en realidad acusando de no haber hecho algo mi actuación fue acorde a mi responsabilidad y en el marco de la más estricta legalidad

de su pregunta que la persona de referencia declaró que conseguir ventajas ilegales es lo que usted no ha dicho ahora conseguir ventajas ilegales

es innegable que la empresa no logró lo que pretendía precisamente

es el mejor exponente de que en euskadi no hay ninguna puerta correcta para conseguir ventajas ilegales las instituciones actuaron con total rigor exigieron al empresario que devolviera toda su deuda a la hacienda pública

se encuentra en la actualidad visto para sentencia como consecuencia de la actuación institucional eskerrik asko

señor erkoreka le hemos hecho una pregunta el grupo socialista estamos

del gobierno vasco en relación con lo que acabamos de conocer sobre el cupo como usted sabe en los presupuestos generales del estado en la previsión para el año dos mil catorce hay mil quinientos veinticuatro millónes de euros a pagar de cupo

en la actualidad en el año dos mil trece no hay explicaciones de por qué ha ocurrido esto no sabemos si es que

en común se han duplicado de precio no sabemos si es que el señor rajoy tiene pocos frentes abiertos en españa

y que hemos tenido un maltratamiento en los objetivos de déficit donde podríamos haber ido a más gasto hemos sufrido estamos sufriendo

por primera vez de una forma extraordinaria se nos ha sacado de los presupuestos generales del estado porque el país vasco no está en el proyecto de presupuestos generales del estado actual

muchos esfuerzos y tiene muchos problemas y muchos frentes abiertos es importante que este parlamento y que la ciudadanía sepa cuál es la hoja de ruta de este gobierno

del país vasco cómo va a defender la capacidad de financiación que necesita este país como hasta la fecha no ha habido una iniciativa de ustedes que nos haya aclarado esta
situación es por lo que le hacemos esta pregunta eskerrik asko prieto jauna erantzuteko

señoría el gobierno está desplegando según su pregunta un conjunto de acciones

por la ley de concierto económico la ley del cupo y la ley de aportaciones el cupo está estructurado y regulado en la espina dorsal de la ley del concierto económico y aspectos puntuales del cupo se desarrollan por una legislación específica que se llama la ley de metodología y de aportaciones al estado por la escala no asumida que es la ley del cupo bien lo que estamos haciendo usted comprobará

una defensa de lo que es el concierto económico y la especifidad dentro del concierto de lo que es el cupo y es que los vascos aportamos a las cargas no asumidas del estado en base a la renta estamos aportando en base a la renta tal como se establecen los parámetros también internos en los que los territorios aportan también a las instituciones comunes en ese sentido yo creo que hay un debate abierto en el estado sobre la financiación de las comunidades autónomas que en algunos

han puesto en tela de juicio incluso pues se habla

imperfecciones que la aplicación práctica que el concierto económico puede suponer y nosotros y fruto de ello es la reciente resolución en esta cámara que se aprobó en defensa del concierto

y en esa línea yo le puedo decir que apolíticamente hemos actuado en esa manera desde el ámbito de lo institucional le quiero

y es que la cifra que usted ha hablado de mil quinientos veintisiete es la estimación que hace el estado como todos los años

hace una estimación del cupo el consejo vasco de finanzas a la hora del cálculo de las aportaciones para el ejercicio dos mil catorce también ha hecho una estimación se lo anticipo

en base a los cuales las cuatro instituciones que conformamos el consejo llegamos a un acuerdo al respecto y por lo tanto hicimos ese cálculo del cupo y luego efectuamos el reparto

también en esa manera el estado tiene sus parámetros siempre ha sido así y la comunidad autónoma con las cuatro instituciones presentes en el consejo de finanza acordamos

las diferencias que puedan existir han sido las habituales que puede haber

a través del diálogo que es como debe de resolverse las cuestiones políticas y más en concreto

estamos manteniendo y en esa línea de trabajo vamos a seguir trabajando nada más eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna prieto jauna zurea da hitza

sino le estoy haciendo un emplazamiento político algo que es mucho más importante

y es saber cómo va a defender el gobierno del que usted participa a la ciudadanía vasca en un momento en el que se están haciendo verdaderos esfuerzos por parte de los ciudadanos

a pedir a muchos ciudadanos y ciudadanas que aporten más que se esfuercen más y cuando sin embargo por otro lado por una de las vías de financiación que es fundamental para que este país y este gobierno pueda ejecutar políticas económicas y sociales

cada dos por tres ya sé que ustedes se exhiben últimamente muchas reuniones unas secretas

muchos acuerdos mucha sintonía los analistas se hacen eco de esto entre el partido nacionalista vasco y el partido popular entre el gobierno vasco y el gobierno de españa pero no vemos en qué se materializa eso no vemos en qué se concreta vemos como euskadi se desangra vemos como

vemos como los elementos económicos y sociales de este país van mucho peor que los de territorio común vemos como se pide esfuerzo a la ciudadanía

esa sintonía ese acuerdo ese buen rollito entre el partido popular de españa y el partido nacionalista vasco en relación con los problemas que tiene euskadi y antes le he citado estamos siendo maltratados en el aspecto de los objetivos de déficit

en las consignaciones en los presupuestos generales del estado se han paralizado las inversiones

además tenemos esta nueva amenaza de que lo que figura el estado como nuevo

no es que sea una cosa solo unilateral es que luego tiene resortes y mecanismos utilizar y bloquear otro sistema de financiación o de compensación con el país vasco a todo esto es a lo que yo le pido mi grupo le pide explicaciones dónde está esa solvencia

los indicadores de la economía vasca no son peores que las de territorio común ni en renta

ni en tasas de paro los indicadores de la economía vasca es una economía que tienen unos indicadores mejores en todos los conceptos que le he dicho en cuanto al tema del maltrato mire usted nosotros hemos llegado a un acuerdo

un acuerdo supone una concentración y conciliación de voluntades entre la administración general del estado y la comunidad autónoma y por lo tanto en estas cuestiones institucionales el acuerdo es la base de la política y el acuerdo en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera da unas oportunidades a este país

que hay que mantener entre instituciones de poder posibilitar también la financiación y la estimulación de nuestro tejido económico a través de unas modalidades financieras de inyección de liquidez a las pequeñas y medianas empresas del país a través de los recursos que también aporta la unión europea a través de su

con el estado cuando usted me dice que a ver por qué no se está solucionando mire las discrepancias en estas cuestiones que además de la complejidad política que no tengo más tiempo en profundizar

muy buenos días señorías lehendakari cómo nos está costando asumir

y venimos de una semana especialmente crítica lehendakari una semana en la que hemos podido comprobar la cruda realidad esa cruda realidad

de ese realismo ante un mundo abierto un mundo más competitivo también aquí en euskadi y tenemos dos opciones ante esta cruda realidad

de una realidad dolorosa que afecta a empresas que han sido buque insignia de nuestro país o empezar a espabilar

que solos no vamos a ninguna parte y decirles la verdad decirles que no podemos vivir

de tiempos pasados que todo eso se acabó lo más importante hoy lehendakari en política es que los gobiernos aquí allí en españa en reino unido en estados unidos también

lo más importante como le decía es decir que nos hemos quedado sin dinero como los ciudadanos tenemos unos déficits presupuestarios

aumentando y eso nos lleva a reconocer algo muy sencillo que debemos mejorar las cosas sin gastar más dinero y eso es difícil lehendakari esa es nuestra obligación esa es su obligación gestionar desde la escasez y decirlo claramente lehendakari después de pasarse una legislatura entera criticando el endeudamiento al que por cierto nosotros pusimos límites en muy pocos meses ustedes su gobierno ha incrementado ese endeudamiento en mil setenta y nueve millónes de euros y yo le pregunto piensa usted

no podemos vivir en la abundancia la referencia al déficit me puede decir usted desde el discurso de investidura en el debate de investidura

he dicho sobre la cruda realidad he hecho referencia sobre la cruda realidad sobre la manera de gestionar que va a tener este gobierno y que está teniendo este gobierno con planteamientos de los que yo mismo he sido el principal referente en cuanto a lo que es la situación señora quiroga

constante a la deuda usted me lo pregunta

usted ha apoyado en esta cámara los presupuestos del gobierno anterior que apeló a la deuda pública de forma constante señora quiroga no dijo una palabra cuando el gobierno anterior

aprobó un déficit y luego lo superó no dijo usted una palabra votó esos presupuestos con déficit y aprobó su liquidación

no dijo ni una palabra cuando el gobierno anterior inició su andadura con una deuda

y la dejó por encima del diez por ciento tres años después

dentro de cuatro años la deuda en euskadi se podría situar en el noventa por ciento

es como se encuentra la deuda en españa con el gobierno de su partido eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

lo que le estoy diciendo es algo tan sencillo como que si

ponga en marcha las medidas usted

un plan realista y que sea eficaz

lo están haciendo y su gobierno han pasado ya de los discursos a los hechos yo le he dicho los datos lo que hemos venido

ya estamos en el doce coma ocho por ciento del producto interior bruto en deuda y qué va a hacer es que usted tiene ahora la responsabilidad

a la historia como el lehendakari que tiene que dedicar más dinero a pagar la deuda y eso es deuda para el futuro por eso lehendakari lo que le ofrezco es

un plan para reducir el gasto público en dos años y pasar a siete mil doscientos millónes

y en diez años reducir la deuda pública a dos mil quinientos millónes de euros

propuestas concretas que vayamos a acordar lo esencial y lo esencial es esto que no dejemos hipotecadas a las generaciones futuras nuestro país porque eso es lo que va a hacer que no salgamos de esta oportunidad que tenemos ahora

actuaciones y le pido que la misma exigencia que tiene hacia los demás la tenga hacia su propio gobierno

señora quiroga insisto el gobierno anterior con su total apoyo a críticos sí señor quiroga gastó cada año más de lo que tenía el gobierno anterior

usted lo apoyó lo votó no lo impidió en ningún momento

señora quiroga de su ejercicio de responsabilidad durante la legislatura pasada también

que el partido popular y el partido socialista se vieron obligados a aprobar una modificación de la constitución en pleno mes de agosto para evitar

se siguiera haciendo crecer la deuda sin control ese es el contexto en el que estamos viviendo ahora también

para evitar que nadie más hiciera lo que ustedes hicieron durante tres años señora quiroga ustedes también ustedes señora quiroga

ustedes lo hicieron tanto que se lo tuvieron que prohibir a sí mismos

hoy el gobierno vasco actúa con rigor

y se cumplen le suena a usted algo la consolidación fiscal a la que ha procedido este gobierno le suena a usted algo la disciplina presupuestaria con la que estamos

están acordados señora quiroga con el gobierno español

están acordados y firmados el doce de septiembre pero en cualquier caso sabe usted por qué endeudarse hoy euskadi en muy buena parte porque tenemos que pagar ahora los intereses y las amortizaciones de la deuda del gobierno anterior que usted aprobó señora quiroga este año han sido cuatrocientos cuarenta y ocho millónes

este gobierno señora quiroga ni está gastando ni va a gastar más de lo que tiene y esto es lo que no ocurrió en los ejercicios

y dos mil once de lo que ahora y para el futuro trae causa

señores consejeros señor lehendakari usted y el diputado general de bizkaia mantuvieron esta semana pasada una reunión en nueva york con responsables de la fundación solomon

usted explicó que se trataba de una reunión de cortesía pero con contenido nosotros queremos saber cuál fue el contenido de esa reunión de qué hablaron qué posición fue la que defendió usted en aquella reunión

histórica estratégica por otro lado el trece de junio de este mismo año el pleno del parlamento vasco aprobó la siguiente enmienda de transacción con el único voto en contra del grupo nacionalistas vascos el parlamento vasco asume las consideraciones y recomendaciones

para el análisis y la evaluación de la trayectoria del museo guggenheim e insta al gobierno vasco a que las incorpore como propias en el proceso de conformación de la posición vasca de cara a la negociación con la fundación americana para el acuerdo de gestión que deberán firmar en diciembre de dos mil catorce desconocemos

por las instituciones vascas desconocemos si usted defendió las consideraciones y las recomendaciones del dictamen de la ponencia parlamentaria

usted ahora explicarnos nosotros le preguntamos cuál fue el contenido de esa reunión y si efectivamente usted defendió las recomendaciones que realizó aquella ponencia

parlamento si hicieron suyas las consideraciones y las recomendaciones de la ponencia parlamentaria si lo han hecho si lo hicieron en esa reunión o si lo van a hacer

introduce usted señor maneiro en la justificación en comparación con la pregunta siguiente y con la interpelación posterior que sobre el mismo tema tengo a citar que como usted ha dicho esta ha sido la primera ocasión en que el diputado general de bizkaia y el lehendakari han acudido juntos a una reunión

otro viaje del entonces lehendakari ardanza y el entonces diputado general

y ha hecho referencia usted es cierto no sé si el hecho merece el calificativo de histórico pero sí que simboliza el camino que pretendemos recorrer juntos y para ello estamos trabajando la diputación foral de bizkaia y el gobierno vasco primero en primera instancia como instituciones vascas

sirvió para poner de manifiesto la unidad de criterio necesaria para que este proyecto desde lo que es la representación de las instituciones vascas

pueda seguir creciendo en el ámbito internacional tras la renovación del contrato

lehendakari las reuniones de cortesía pueden tener cierto sentido pero

tenía que haberse basado en lo que este parlamento le exigió a usted

lo que esta ponencia parlamentaria lo que este parlamento vasco le exigió al actual gobierno vasco y nos parece correcto que así sea y nosotros se lo volvemos a exigir que este

asuma las consideraciones y las recomendaciones de esa ponencia pero creo que

podían haber empezado ya a defender lo que esta ponencia parlamentaria recomendó a este gobierno

yo quiero aclararle porque yo trabajé a fondo con otros parlamentarios vascos en esa ponencia queremos aclarar al gobierno vasco y a la ciudadanía para que no haya ningún tipo de duda que esa ponencia en ningún momento cuestionó el extraordinario éxito que el museo guggenheim ha tenido para bilbao y para el país vasco en ningún caso y creo que el gobierno socialista anterior tampoco tampoco se puso en duda

quieren en fin lanzar esa idea de que esa ponencia parlamentaria trató de criticar o poner en cuestión un éxito que es absolutamente indudable por lo tanto le pido que efectivamente en el futuro usted y ustedes defiendan las recomendaciones el total de las recomendaciones que esa ponencia planteó que creo que me imagino se las habrá estudiado a fondo y lo que básicamente defiende en fin un contrato más equilibrado en la toma de decisiones y no en régimen de franquicia entre la administración vasca y la fundación americana creo que es lo que más interesa a los bilbaínos a los vizcaínos y a los vascos y creo que está en su obligación

defienda esa posición que además tiene que ser común tal como usted

en mi caso como lehendakari una visita de cortesía porque no era el motivo central del viaje a estados unidos del lehendakari

pero ya que estábamos allí y tratando que tenemos que proceder a una negociación con la fundación solomon guggenheim es bueno también que primero habiendo habido cambios en el patronato de la fundación solomon guggenheim no en el guggenheim bilbao sino en la fundación solomon guggenheim habiendo habido cambios también en el pasado

también con una visión de lo que había sido el proceso de la ponencia

de sintonía de unidad para lo que pueda ser la negociación negociación que abordaremos con

y con la esperanza de que podamos llegar a su conclusión a buen término en primavera del año que viene y negociación que comenzaremos

el próximo dieciocho de noviembre que es para cuando convocaremos el patronato en todo caso quiero cerrar esta intervención haciendo un reconocimiento expreso también del gobierno vasco a las personas que han hecho posible la realidad del guggenheim a las personas que adoptaron las decisiones que han conducido este proyecto a las profesionales que han

a los patronos que hicieron la apuesta por el proyecto y a los amigos del museo en aras a lo que pueda ser

y nos centremos en la negociación isiltasuna mesedez del guggenheim bilbao con la fundación solomon

comencemos por despejar el campo afirmo que los socialistas creemos

es un museo particular y que su efecto ha sido extraordinariamente beneficioso a distintos niveles económicos

culturales y de proyeccióninternacional de bilbao y del país así que mi intervención apuntará a proponer las mejores condiciones para la renovación del acuerdo

qué piensa hacer usted lehendakari porque todavía no lo sabemos ese beneficio indudable que ha tenido el guggenheim para bilbao y para euskadi

también ha sido un gran beneficio para la fundación solomon que no ha logrado extendersu modelo de franquicia

o brasil entre otros y que ha cerrado sedes como la de berlín

es bilbao por lo que no somos la parte débil de la negociación y aunque solo fuera por eso no debiéramos aceptar el actual desequilibrio a favor de la fundación solomon en el poder para tomar decisiones debemos abordar la negociación para la renovación del acuerdo partiendo de la idea

y a nosotros que no se vayan pero así en un plano de igualdad y sabiendo que esto es un juego de intereses en el que no tenemos que entregar la posición desde el principio

basta con repasar algunos aspectos del acuerdo que sustenta el procedimiento de gestión hasta hoy

dirige el museo en su conjunto de hecho el acuerdo dice que la administración vasca acepta que la fundación solomon administrará y dirigirá el museo por un periodo inicial de veinte años también dirigió el conjunto de las obras de construcción del edificio

la gestión de las colecciones y de la programación artística sin olvidar

que se hace a propuesta de nueva york de hecho el guggenheim de bilbao

del museo el proceso vamos a recordarlo porque es interesante la tenedora que está formada por las dos instituciones vascas paga las adquisiciones

la hace la guggenheim de nueva york en conjunto el gobierno vasco y la diputación foral aportan anualmente desde los inicios entre seis y siete millónes al guggenheim parte de los gastos de inicio de marca de funcionamiento queda claro entonces que las administraciones vascas no se reservaron más protagonismo que el de pagar factura por eso la pasada legislatura a iniciativa socialista sí una ponencia parlamentaria trabajó muchos meses con directores de museos exconsejeros

entre otros para analizar y evaluar la experiencia del museo guggenheim

las recomendaciones que hizo la ponencia parlamentaria que fueron respaldadas ampliamente por esta cámara y después aprobadas por unanimidad

y yo no le propongo hoy más que eso que puede resumirse en tres aspectos uno la necesidad de abandonar el carácter de franquicia que de hecho

reequilibrar las capacidades de actuación de cada parte y el tercero implicar más al guggenheim bilbao en la política cultural del país vasco y en su relación con otros agentes culturales lehendakari comparte usted estos objetivos se lo pregunto

o no concretan por ejemplo el pasado marzo la consejera de cultura me respondía que el dictamen aprobado por el parlamento vasco la pasada legislatura es una aportación a integrar en un proceso más amplio de evaluación del museo guggenheim aquí todo son procesos y añadió otras vaguedades pero ninguna concreción

ninguna concreción sobre las intenciones ningún compromiso con las resoluciones parlamentarias

cuando su grupo parlamentario votó en contra de una transaccional entre el grupo popular y el grupo socialista el pasado junio hace solo cuatro meses por la que este parlamento

instó a su gobierno a que incorpore como propias esas resoluciones para conformar la posición vasca

por eso le interpelo hoy y pregunto qué va a hacer usted

en su negociación con la fundación solomon en relación a la defensa de las conclusiones de la ponencia parlamentaria del año pasado sobre la renegociación del acuerdo del museo guggenheim bilbao lehendakari es fundamental que la negociación que acaba el año que viene otorgue más fuerza y autonomía a la parte vasca pero para eso hay que sentarse

y negociar para defender los intereses de las instituciones vascas y le confieso que no lo veo claro porque ni los contenidos de su visita a estados unidos

dan confianza en ese sentido no he leído declaraciones suyas de este lunes en las que asegura que su presencia

no ha sido más que para tranquilizar a la fundación porque este tenía inquietudes respecto a la prórroga de este acuerdo

en el punto anterior ha concedido usted mucho de entrada para empezar

que piense en acercarse a las posiciones vascas para salvar la negociación sobre todo si el museo de bilbao es el único que les da alegrías no es mal comienzo en una negociación que la otra parte no esté segura

o es que usted ya se ha entregado y da por bueno cualquier resultado con tal de no molestar a los americanos

basa su inquietud en que no le gustó la ponencia parlamentaria claro no le gusta porque sus conclusiones buscan modificar

vascas y él trata de evitarlo alarmando con su inquietud y usted se alarma

porque él sí tiene claro que está en una negociación económica y juega sus cartas y nosotros lehendakari qué carta jugamos

cuestionó el compromiso de las instituciones vascas con nueva york

en vez de defender la necesidad de reequilibrar la situación y según usted

los socialistas no desde luego pero en cualquier caso cómo puede decir que eso muestra un sentimiento de localismos o territorialitis usted

para explicar a los congresistas la aspiración de los vascos a tener un modelo de estado diferente

volvemos a los viajes en los que un lehendakari vende el proyecto nacionalista

a ayudar a la expansión de nuestras empresas que es lo que nos dará o no de comer

en fin lehendakari termino reafirmando que los socialistas

apoyaremos o ayudaremos en lo que sea necesario para lograr un buen resultado para euskadi en esta negociación y tenga en cuenta que el éxito de su intervención se medirá por la modificación del estatus actual de forma que sin abandonar la faceta internacional no queremos

la vasquidad del museo a lo que no se opondrá gracias

legebiltzarburu andrea eskerrik asko señor reyes me voy a centrar en la cuestión no voy a entrar en las demagogias a las que ha procedido mezclando intervenciones ante los medios de comunicación haciendo referencias a otras cuestiones hablando de nacionalismo dejando de hablar de lo que es la

mire el ejemplo más patente de lo que pueda ser la apuesta por la internacionalización

reunión a la que procedimos y no creo que en eso haya ninguna tampoco tacha en lo que desde el nacionalismo podamos estar haciendo para la proyección internacional de euskadi

una de las recomendaciones o de las consideraciones recibidas básica a mi entender señor reyes es la que estoy insistiendo indica que la desunión entre las administraciones vascas

la desunión entre las instituciones vascas usted ha hecho referencia a la aceptación por unanimidad de las juntas generales del territorio histórico de bizkaia de las conclusiones de la ponencia parlamentaria en la legislatura pasada por lo tanto

mi intención es poner el foco en esta recomendación de la actuación conjunta de las instituciones vascas que considero fundamental de cara a lograr una renovación satisfactoria del acuerdo comparto esta idea debe evitarse la desunión y disparidad de criterios entre

en la medida de lo posible el gobierno vasco y la diputación foral de bizkaia ya estamos trabajando juntos las dos instituciones vascas hemos trabajado juntas

juntas nuestro objetivo prioritario es tal y como indica la resolución solucionar las discrepancias para unificar criterios primera cuestión somos conscientes

nuestras decisiones desde las instituciones vascas desde el consenso somos conscientes de la necesidad de que la administración vasca tenga

en la gestión del museo guggenheim bilbao compartimos también el objetivo de lograr una mayor proyección y difusión

y del arte vasco en particular de la mano de la fundación guggenheim y trabajamos también y vamos a seguir comprometidos en la ampliación de la red de alianzas del museo y desde luego compartimos que resulta positivo plantear una reflexión

sí señora presidenta bien

para dejar un buen sabor de boca porque es donde podemos encontrarnos pero no puedo obviar por dónde ha empezado ha hablado de demagogias y es una palabra muy fea en política sobre todo cuando alguien se plantea

para citar informaciones publicadas dichas por usted que no ha negado y la conclusión es inmediata es evidente es decir si usted

quita valor al parlamento vasco a las conclusiones de la ponencia del parlamento vasco en en otro país para buscar esa consideración favorable de los americanos lo ha hecho le acabo de leer entrecomillados declaraciones públicas

pero en la respuesta anterior apuntó usted algo de eso también al señor maneiro cuando dijo

es decir está claro que ha habido actuaciones ante la fundación solomon y luego declaraciones a la prensa salvo que el país el mundo

faltando a la verdad o deformando esa realidad está publicado pero sigo diciendo que por lo tanto no solo no son demagogia sino que

en vez de razonar apele usted a ese calificativo porque usted

es mi lehendakari tiene el respeto que le corresponde por el cargo y el señor urkullu tiene mi respeto personal

defendiendo el país claramente sobre todo fuera de él no minusvalorando las conclusiones de las instituciones

aclarándolo pero no diciendo que es demagogia cuando se ha dicho lo que se ha dicho mire lehendakari yo quiero que usted venda el modelo vasco en estados unidos sí

por todo el mundo modelo vasco nuestra universidad

pero en un viaje de acompañamiento escueto

pero el acompañamiento escueto en cuanto a lo que más importa

a los empresarios viajando con usted para acercarse a empresas con su mediación sí ha estado usted reunido para

y airea nuestros problemas en el extranjero y para un proceso que no acabo de entender ahora mismo tiene que ver nueva york o nuestra imagen en nueva york

entonces el modelo de euskadi que yo espero que venda es el modelo de la competitividad de un país abierto de un país que merece la pena visitar pero no un modelo

después del final del terrorismo en cuanto

coinciden en parte con lo que se recoge en las conclusiones de la ponencia autonomía de gestión

más exposiciones individuales de artistas vascos y promoción en el exterior del arte vasco algún sitio para tener ubicadas obras de artistas vascos en sitios particulares del museo racionalizar la organización interna que racionalizar es lo único

racionalizar puede ser solo modificar la definición de puestos de trabajo va a haber un director artístico que permita

tener un criterio en euskadi para decir eso nos viene bien o no es adecuado o no para una colección que también él debería de ayudar a definir permanente con una coherencia en euskadi vamos a decidir sobre la compra porque ahora propone la fundación

y da el visto bueno y nosotros compramos y pagamos qué significa

dos puestos de responsabilidad incompatibles al menos en una negociación uno en bilbao y otro de ámbito global en la fundación solomon

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor reyes ha dedicado media parte de su intervención en esta segunda intervención
a hablar de la demagogia usted ha vuelto a mezclar

no tomando la referencia de lo que fue mi intervención exacta el día de la reunión en el

con la fundación solomon guggenheim señor reyes le apelo a que tome usted la referencia exacta de lo que dije en la fundación

desde luego puede estar usted absolutamente tranquilo en la defensa del modelo vasco que yo haya podido hacer en estados unidos

en un vuelo charter no hace falta viajar con una delegación empresarial para encontrarse allí

y mantener el encuentro pertinente no hace falta viajar en un vuelo charter con empresarios vascos

la posible implantación de nuevas empresas vascas que tendrá su colofón también con la visita

en todo caso centrándome en lo que es el guggenheim señor reyes puedo garantizarle que es una prioridad la renovación del acuerdo guggenheim y lo es para las dos partes y las reuniones de trabajo que hemos mantenido creo que han sido fructíferas en lo que pueda ser el establecimiento de una base para ese entendimiento entre dos partes lo primero es lo que he defendido

representación de las instituciones vascas en mi primera intervención señor reyes he citado los objetivos que nos planteamos en el proceso de renovación del acuerdo con la fundación guggenheim

pero me va a permitir que destaque uno por encima de todos quiero destacar en su integridad

me va a permitir dar lectura a esta valoración del museo guggenheim bilbao recogida y suscrita por la propia ponencia

en la transformación urbana de bilbao y en la revitalización económica urbanística social

los informes económicos realizados por guggenheim bilbao museoa y la opinión generalizada de los comparecientes destacan el éxito del museo como tractor del sector turístico en bilbao

de ahí la referencia posterior a evitar lo que puedan ser territorialitis y localismos en relación a que es un proyecto no solamente de bilbao

creo que todos y todas el mismo partir con esta base común creo que despeja el horizonte nos encontramos ante una experiencia de éxito es indudable la propia ponencia reconoce que guggenheim bilbao constituye una experiencia exitosa para euskadi

y nuestra obligación es contribuir a que esta experiencia se vea ahora

de cara a los veinte años siguientes si fuera necesario es cierto que hace veinte años guggenheim bilbao era una incógnita y que las condiciones en el acuerdo de gestión fueron unas hoy es una certeza y las condiciones en lo que pueda ser la negociación para la prórroga del acuerdo de gestión tienen que ser otras y yo atenderé especialmente lo que hayan sido las recomendaciones de la ponencia parlamentaria en la legislatura pasada señor reyes téngalo usted bien presente y además lo han dicho anteriormente

en orden a lo que es la propia ponencia no

en la legislatura pasada fue la trascripción de lo que fue

que el proyecto guggenheim bilbao tiene la consideración de experiencia exitosa en el mundo yo no diría que es el único que le da beneficios a la fundación guggenheim en estos momentos otra cosa sería

del museo guggenheim nueva york tampoco en estos parámetros

creo que ha servido para recuperar la confianza en lo que pudieran ser las dudas de los cambios habidos en el patronato

y no en lo que respecta a la ponencia sino en declaraciones que se habían hecho también en cuanto a la posibilidad de la retirada de la marca guggenheim

esas declaraciones en todo caso mi compromiso el de las instituciones vascas el de los patronos y el de la fundación es proceder a una renegociación

resulta que este año el ministerio de hacienda se encuentra con la necesidad de hacer frente a un déficit de tarifa eléctrica muy importante de tal forma que lo que hace es

parte de ese déficit lo asume desde los presupuestos generales del estado parte los asumimos entre todos los consumidores privados

y otra parte carga sobre las industrias y en este caso alrededor de novecientos millónes de euros quizá

es que además de ese cargo de los novecientos millónes de euros directo sobre empresas en la mayoría pymes en euskadi sin duda el que dos mil setecientos millónes aproximadamente vayan sobre las compañías eléctricas

en euskadi hace que precisamente no se produzcan nuevas intervenciones modernizaciones que en definitiva van en encargos de nuestras empresas luego además de la situación de partida que teníamos le sumamos los novecientos millónes y además nuestras empresas no participan en esa modernización es una decisión en definitiva que nos aleja de una política industrial seria

más allá de criterios estrictamente financieros y que desde luego en francia o alemania como decía

provocan una pérdida importante de competitividad de nuestra industria

de aproximadamente un siete coma cinco por ciento y se ha comprobado que en euskadi como mínimo es un veinte

nolabait konpontzeko pedimos en primer lugar dar seguridad retributiva a la cogeneración industrial

porque estamos ante un sistema eléctrico con unos sobrecostes impresionantes y que tienen su reflejo en ese llamado déficit tarifario que es la parte regulada de la tarifa eléctrica que pagamos todos y todas

está por ejemplo la moratoria nuclear eso a modo de ejemplo porque no es el mayor valor de ese déficit tarifario

a una serie de empresas por una apuesta que hicieron por un modelo insostenible empujadas por partidos como por ejemplo el partido nacionalista vasco pero el mayor coste de ese déficit tarifario

y baja tensión de un modelo centralizado en la producción que aleja los centros de producción del consumo y que necesita una red de trasporte y distribución totalmente ineficaz

electricidad y por lo tanto genera un gran sobrecoste y además también porque hay que bonificar en el año dos mil trece a las energías

modos de producción de energía eléctrica porque ese sistema eléctrico no tiene en cuenta los costes medioambientales de fuentes de energía como el carbón la nuclear o el gas ese es un sistema enfermo que tiene que

a las energías renovables es un sistema enfermo por lo tanto para nosotros y nosotras ahí está la clave intentar cambiar

eléctrico hacer un modelo mucho más distribuido acercando los puntos de producción y los puntos de consumo y eso se consigue con una apuesta por las energías renovables

pensamos que hablar simplemente de medidas financieras o contables como pueden ser bonificaciones o dar ayuda técnica a una serie de empresas

eléctricos son tiritas cuando el verdadero problema es el modelo eléctrico español y tendremos que ver

desde euskadi para poder tener un modelo eléctrico diferente por lo tanto eso es lo que le pedimos a un gobierno que además de poner tiritas que en un momento concreto
puede ser adecuado para salir del paso lo que tiene que hacer es poner medidas curativas no solo paliativas eskerrik asko eskerrik asko

el problema es de fondo ahora bien usted no hace una consideración y es que el problema está en como se han tratado las energías renovables en el sistema no en nada del resto en las energías renovables

con la solar no lo hemos hecho y sigue siendo absolutamente deficitaria ahí está el quid de la cuestión

y a que sea competitiva esa va a ser la solución eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera

gracias señora presidenta egun on señoras y señores parlamentarios señor lehendakari la verdad es que es la tercera pregunta o la tercera cuestión

lo cual constata la importancia del tema las dos anteriores intervenciones la pregunta del señor maneiro la interpelación del señor reyes bien han sido

buenos momentos para conocer la situación nosotros queremos que esta pregunta

para ayudar al gobierno para ayudar a la parte vasca

con la renegociación con la negociación a que se aborda que según parece no ha empezado todavía con la parte pero que creemos es importante hay que

hay que desear éxito en la negociación a la parte vasca y hay que entender que las conclusiones de la ponencia parlamentaria fueron importantes es decir que ese trabajo el trabajo que hizo esa ponencia parlamentaria que quiero

la señora corrales el señor maneiro y yo mismo hizo un trabajo concienzudo

entre el parlamento y la parte vasca va a ser importante para la negociación en las claves que

deban de ser así usted ya ha hablado de ello y le agradecemos además porque hemos visto

nosotros temíamos y hemos visto con preocupación determinadas desconfianzas recelos en la actitud del grupo nacionalista desde el inicio de los trabajos de aquella ponencia y hemos visto que

declaraciones y después de las palabras que ha dicho el lehendakari parece que se despeja

sirva esta pregunta que le hacemos pues para tratar de que

que el parlamento y el gobierno debe hacer para dar fortaleza a esa renegociación y negociación que tiene que ser así que tiene que fortalecer

después de veinte años de trayectoria y en ese sentido pedirle respuesta a esta quizá no tanto pregunta o esta reflexión que con posterioridad

señor barrio en mi respuesta anterior me he definido con claridad la posición del gobierno vasco en relación a la renovación del acuerdo de gestión con la fundación y no tenga ninguna duda señor barrio yo tengo el informe de la ponencia de la legislatura pasada lo tengo lo estamos trabajando desde el departamento de cultura la propia consejera el viceconsejero de cultura el director de patrimonio

política lingüística y cultura y yo mismo lo estamos trabajando y lo tenemos muy presente a la hora de plantear la negociación primero insisto en la búsqueda de una sintonía absoluta con la diputación foral de bizkaia como estoy seguro de que será me preguntaba o me planteaba usted

y yo se lo agradezco y desde luego tenga usted presente también que este lehendakari y el gobierno vasco

lo que hayan sido las recomendaciones las conclusiones las diecinueve que antes en lo que ha sido la respuesta en la interpelación al señor reyes

epígrafes fundamentales en todo caso insisto este objetivo de negociación y tomando en consideración como he dicho reiteradamente

estarán sobre la mesa del patronato que se celebrará el próximo día dieciocho de noviembre en bilbao eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gracias señora presidenta señor lehendakari pues también agradecerle su respuesta y la vinculación sobre todo es decir

de una manera yo creo que saludable para esta negociación además es que dentro del plan estratégico dos mil trece dos mil catorce del propio museo se contempla la madurez adquirida ya por el propio museo y describe su relación

oportunidades de mejora para la parte vasca en relación con ese proyecto exitoso que ha sido el guggenheim y que lo sea y que se materialice así durante veinte años más ha habido algunas declaraciones que también han sido significativas y que agradecemos es

esa vinculación a los objetivos de la ponencia que desde un principio tuvimos claro que era claro lo que había que hacer el acierto de lo que iba a ser la negociación el objetivo es crecer

artística que redunde en la cultura vasca eso lo dijo bilbao el señor bilbao y efectivamente

es esa definición para mejor de la cultura vasca y el arte vasco algo que queda pendiente

la definición de la cultura del arte vasco y esa proyección esa internacionalización del mismo con una garantía que hasta ahora

las diecinueve conclusiones o las diecinueve recomendaciones de la ponencia parlamentaria sentido también la referencia que usted ahora hace poniendo en boca

nuestra apuesta por el crecimiento también de la presencia del arte vasco en lo que pueda ser

bilbao insisto nuestro encuentro con la fundación en nueva york tanto

de seguir compartiendo esta experiencia de éxito que tiene un reconocimiento internacional yo creo que es una prioridad la renovación del acuerdo guggenheim en base también a lo que pueda ser el análisis de estos veinte años pasados y creo que lo es para las dos partes

una gran sintonía en los objetivos y el reto que creo que tenemos nosotros y nosotras es el reto del nuevo acuerdo y es

referencia y las oportunidades que guggenheim ofrece en euskadi

la ponencia parlamentaria a mi juicio las reconoce y a nosotros nos corresponde aprovecharlas a los representantes de las instituciones vascas nos corresponde

reitero que para nuestro gobierno es una prioridad la renovación de este acuerdo vamos a trabajar con este objetivo para lo que ha sido bueno para el país

adecuado a las circunstancias actuales veinte años después de una experiencia de un acuerdo de gestión que surgió en unas condiciones determinadas y que hoy las condiciones son otras también para la fundación solomon guggenheim

también para el museo guggenheim bilbao también en relación a lo que es esa

en una red global en la que tenga que participar eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamargarren puntua galdera

egun on guztioi señor lehendakari usted como se ha dicho esta mañana y ya sabíamos se ha ido a nueva york se ha ido a estados unidos entre otros sitios a nueva york

más allá de visitas importantes y de

ubicadas allí usted ha dicho cosas ha dicho cosas allí en estados unidos que afectan a euskadi

en euskadi también de cara al futuro y sobre eso queríamos preguntarle esta mañana también

con un senador y cinco congresistas y les dijo que cree necesario para euskadi un nuevo modelo de estado

diferente la pregunta que queremos hacerle señor

es cuál es ese modelo diferente de estado porque si lo afirma en estados unidos sería bueno

cómo han tomado allí su pretensión de avanzar de ir hacia un hipotético referéndum de independencia en el año dos mil quince o el dos mil veinte vaya usted ha saber y cómo se compatibiliza

sea puerta de entrada a europa de inversión estadounidense cuando su pretensión es salir de europa a través de la independencia muchas gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea hombre que la pretensión sea salir de europa

creo que no es correcto decir cuando nosotros estamos diciendo que somos europeos y nuestra apuesta es más europa desde el respeto a lo que puedan ser las aspiraciones políticas ideológicas que nosotros podamos tener y yo perteneciendo al partido nacionalista vasco

y no voy a mezclarme en este debate que ya tuvo su reflejo

usted preguntaba por el criterio del gobierno vasco para seguir ofreciendo internacionalmente puertas de entrada

sémper el gobierno vasco cree que una vía de trabajo importante para la internacionalización de euskadi su economía y sus empresas es ser

de euskadi en las relaciones transatlánticas nos sitúa como puerta de entrada a europa y queremos fortalecer esa posición

lo que he defendido una y otra vez en los encuentros también de carácter político e institucional que he tenido en washington fundamentalmente y también el encuentro académico que tuve en la universidad de columbia y también el encuentro que mantuve de carácter económico empresarial con las empresas vascas y con las autoridades locales también

más allá de lo que pueda ser también la referencia al proceso de paz y las aportaciones que al proceso de paz podamos recibir también

en cualquier caso insisto el eje europeo del atlántico

y es deber de los países del atlántico fortalecer ese eje de relación hice referencia a lo que es el acuerdo de

en esa relación bilateral entre estados unidos y la unión europea fíjese señor semper el primer embajador de españa en estados unidos fue gardoqui

quien tuvo una gran influencia además el señor gardoqui durante la guerra de la independencia

el segundo presidente americano john adams visitó euskadi para conocer nuestro sistema político

pero sin embargo alabó las leyes y la democracia de los territorios vascos no sé cuál es el problema en que podamos tener un autogobierno

o que eso pueda ser impedimento para una relación de puerta de entrada de europa o de puerta de entrada de los estados unidos yo la relación de euskadi con estados unidos

hoy estados unidos es el tercer país en exportaciones de euskadi el pasado año alcanzamos

lo que supuso un incremento en las ventas de un cuarenta y cuatro por ciento todo esto es lo que he tenido muy presente

en el viaje a estados unidos y en mis diversas conversaciones que he mantenido con los responsables institucionales empresariales económicos políticos académicos
en orden a lo que es la explicación de lo que es euskadi en estos momentos eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna semper jauna zurea da hitza

porque a pesar de que ustedes están permanentemente con el retrovisor hace doscientos años

de carlos cuarto es decir más implicación con la corona y con la tradición vasca

ese es precisamente el modelo pero es que resulta que usted nos dice exactamente lo contrario

y su objetivo es la independencia de euskal herria eso es una realidad objetiva espero no ofender con esto a nadie el partido nacionalista vasco independentista quiere la independencia quiere la segregación su objetivo político la segregación de euskadi con respecto a españa y eso supone automáticamente la salida de euskadi

bien entonces usted va a estados unidos y se ofrece como puerta de entrada para inversiones norteamericanas en europa alguien cuyo objetivo es salirse de europa

claro cuando alguien busca cuando una empresa cuando un inversor busca un lugar donde precisamente hacer esa inversión adopta esa decisión en base a varios factores

es uno de ellos la situación económica obviamente la seguridad jurídica que ese territorio le ofrece y embarcarnos en una operación como la que ustedes quieren

o como ha dicho en estados unidos en el dos mil veinte no sabemos cuándo nos saca de europa

efectivamente lo bien que lo hacían los vascos en colaboración con el resto de españa claro que sí ya lo sabemos pero es que hay que mirar al futuro también apoyándonos en el pasado pero ustedes apoyan el pasado

porque ese pasado es el que nos ha permitido a los vascos y el que le ha permitido a euskadi unas cotas de autogobierno de bienestar

la ruptura la segregación el lío la bronca

la independencia nos aleja a los vascos del progreso nos aleja de europa y desde luego no atrae ninguna inversión aclárense y sobre todo no nos líen no a nosotros sino al conjunto de los vascos muchas gracias

a la soberanía más plena posible a la soberanía más plena posible de los vascos y vascas y en orden a lo que pueda ser un desarrollo de un autogobierno que redunde en un bienestar para los vascos y vascas

le vuelvo a decir que queremos ser referencia en europa en las relaciones internacionales queremos ser y vamos a trabajar para serlo porque como le he dicho en mi primera intervención no veo un escenario diferente
a que euskadi sea europa por mucho que usted se empeñe y no como objetivo sino como castigo eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako

lehendakari yo creo que usted cree en la importancia de la educación en valores

usted que es importante para educar en valores conocer nuestro pasado de violencia y de terrorismo considera usted que es necesario educar en la memoria para construir un futuro con libertad y justicia

de acuerdo en que hay que educar para la convivencia democrática y para combatir la justificación de la violencia y el quebrantamiento de los derechos humanos pues todo eso

todo eso era el compromiso del carlton y eso se ha borrado del compromiso del carlton

díganos lehendakari porque esta no es una pregunta retórica pretendemos mejorar la situación qué piensa usted que gizalegez

qué nuevos agentes ha incorporado gizalegez

y le voy a decir que el acuerdo gizalegez tal y como usted ha dicho no es una sustitución

yo creo que es bueno subrayar la importancia

sindicales y que no incorpora a los agentes sindicales creo que por un movimiento táctico estratégico de alguno de los sindicatos que hasta última hora estuvo en una posición de decir un sí crítico

un no abierto ante lo que era la estrategia de otros sindicatos pero en todo caso yendo a lo que es el acuerdo gizalegez

un paso más un paso más en un recorrido de consenso y acuerdo con la comunidad educativa que viene de atrás que viene de la legislatura pasada y que mira hacia delante

de la comunidad educativa vasca salvo los sindicatos que se pueden referenciar se trata de un compromiso socioeducativo entorno a cuatro bases de educación

el secretario general de paz y convivencia se refirió expresamente

como uno de los antecedentes del acuerdo gizalegez y no por lo tanto con la pretensión de sustituirlo sino como uno de los antecedentes

reunía a la comunidad educativa alrededor de una idea básica que es el respeto y la promoción de la dignidad humana y de los derechos humanos esto fue importante

lo que ocurre es que no tiene una secuencia lógica fíjese usted qué frases qué declaraciones han sido

que es un canto a la tolerancia ciertamente pero que de alguna forma es un documento que ha quedado muy corto muy descafeinado con respecto al primero habríamos entendido la secuencia si hubiera sido al revés es decir si primero hubiera venido sumar restar multiplicar y dividir y después el compromiso del carlton pero fíjese usted qué frases qué declaraciones más

no están impulsar una educación basada en el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona por encima de cualquier proyecto o circunstancia

fomentar una actitud crítica frente a todo tipo de justificación de su violación en el pasado presente futuro promover acciones tendentes a buscar la empatía con las víctimas de la conculcación de estos derechos se han eliminado no hay conocimiento veraz de nuestro presente y nuestro pasado ya no hay memoria y sin memoria como dice el carlton

de encaje muy muy fino pero es que además gizalegez

una reproducción literal en un trozo obviamente del plan de convivencia democrática que todavía no ha sido aprobado oficialmente necesita las aportaciones de esta cámara

porque es muy interesante la incorporación de aquellos tres sindicatos que efectivamente no firmaron el compromiso del carlton pero nunca a costa

un texto de esta naturaleza que costó tanto componer por lo tanto tenemos que trabajar muchos más efectivamente en sumar en multiplicar

tenemos la obligación de darle un eslabón a esta cadena de vincular el nuevo

documento con el antiguo en su debido orden y yo creo que

legebiltzarburu andrea eskerrik asko señora celaá pues precisamente creemos que en estos momentos se dan nuevas condiciones para avanzar desde esta voluntad

en identificar cuatro factores que constituyen causas de ruptura de la convivencia

y que la respuesta preventiva debe articularse alrededor de cuatro conceptos pedagógicos que permiten profundizar en la educación para la convivencia que hay que sumarlos al acuerdo del carlton que hay que ponerlos en otro orden bien

que creo que es necesario subrayar son los siguientes primero convivir es aceptar que nuestras perspectivas son siempre incompletas la experiencia educadora

segundo convivir es aprender a promover las oportunidades entre las dificultades la experiencia educadora del valor positivo previene el fatalismo y

nuestra responsabilidad ética en cada circunstancia la experiencia educadora de la conciencia ética previene el maniqueísmo y promueve la empatía y la solidaridad cuarto convivir es comprender

la experiencia educadora de la dignidad humana previene el recurso a la violencia y promueve el respeto a los derechos humanos gizalegez por lo tanto es un acuerdo que reúne a la comunidad educativa entorno a un compromiso de presente y de futuro poner en común el desarrollo de sus cuatro conceptos educativos junto con el acuerdo del hotel carlton será
un trabajo de modo compartido para acciones humanas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

señor lehendakari le quiero preguntar por

en relación a la custodia compartida a nosotros nos parece ciertamente triste que todo lo que tenga que decir la directora de emakunde en relación a la custodia compartida sea lo siguiente sorprende que padres pidan la custodia compartido tras haberse desentendido del menor me parece que son unas declaraciones que están fuera de lugar y que son claramente injustas

dudas sobre el régimen de custodia compartida creo que la directora de emakunde trató de sembrar dudas sobre los padres que piden la custodia compartida

trató de vender la idea o la sospecha malintencionada de que los padres que piden la custodia compartida se han desentendido ante sus hijos y por esto nos parece que son unas declaraciones que están fuera de lugar y enormemente injustas y por eso le pregunto a usted qué le parecen estas declaraciones

y qué opinión le merece a usted la custodia compartida y si que considera

a los padres y madres en caso de separación tanto en derechos como en deberes gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko erkoreka jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro una recomendación si quiere la toma si no la deja no es aconsejable guiarse

minititulares de los medios de comunicación para formular acusaciones como las que usted hace si quiere saber cuál es la posición de emakunde sobre esta cuestión que plantea en la pregunta le recomiendo que se lea lo que al respecto se pone en la página web de emakunde que dedica

un pequeño titular situado en la parte superior derecha porque sé cual es de un medio de comunicación muy concreto que parece ser su única fuente de información para presentar iniciativas parlamentarias

no es recomendable actuar de esta manera usted plantea una cuestión en la de la guardia y custodia compartida

social mediático institucional notable pero por el modo en el que formula la pregunta me da la sensación

es el que deriva estricta y exclusivamente de lo que está dispuesto en el artículo noventa y dos del código civil concretamente en sus párrafos quinto y octavo porque de hecho se está avanzando ya en la custodia compartida se está avanzando por vía legislativa y se está avanzando sobre todo por vía jurisprudencial

y por vía jurisprudencial porque hay una serie de sentencias del tribunal supremo de los últimos tres años con particular intensidad en los años dos mil doce y dos mil trece consolidando además doctrina jurisprudencial a lo largo del dos mil trece

que prácticamente nadie tiene que ver con lo que se establecía literalmente en el artículo noventa y dos del código civil muy resumidamente esta

el régimen de guardia y custodia compartida no es un régimen excepcional es un régimen más

que es útil sobre todo porque permite a los menores mantener una relación normalizada y razonable con sus progenitores que es lo que se establece

segundo que la guardia y custodia compartida lo debe solicitar

excepto que sea justificado por el interés superior del menor no debe ser acordado por el juez y en tercer lugar

debe hacerse en función sobre todo el interés superior del menor por tanto en la línea que usted apunta se está avanzando ya se está avanzando por vía legislativa y se está avanzando por vía jurisprudencial para todo el conjunto del estado en la medida en que se fija una doctrina jurisprudencial muy clara

que esto ya está resultando irreversible nada más y muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias presidenta en todo caso señor erkoreka la directora de emakunde dijo lo que dijo y seguramente diría más cosas pero dijo también que sorprende que padres pidan la custodia compartida

y no parece que esto sea lo fundamental del asunto hubiéramos preferido que la directora de emakunde y que el propio lehendakari que podría haber respondido a esta pregunta se hubieran mojado más y más claramente en defensa de la custodia compartida como norma preferente evidentemente ha habido avances en los últimos tiempos

si el lehendakari y si este gobierno comparte esos avances y quieren que siga habiendo avances en esta materia para que la custodia compartida sea finalmente

al lehendakari y evidentemente nosotros ya hemos pedido la comparecencia de la directora de emakunde para que próximamente esperemos que cuanto antes pueda comparecer en esta cámara y explique

a este asunto en relación a la custodia compartida porque creo que emakunde debe defender la igualdad entre hombres y mujeres y por esto nos parece un asunto absolutamente capital

compartida y por eso yo le pido al lehendakari le pido

que se comprometa con la defensa de la custodia compartida

y mujeres le pido que se moje al lehendakari y que defienda claramente la custodia compartida preferente evidentemente la custodia compartida respeta mejor el principio de igualdad entre mujeres y hombre elimina las dinámicas de ganadores y perdedores

y contacto directo con ambos progenitores y de modo regular es el sistema que mejor garantizaría una verdadera igualdad de derechos oportunidades y de trato

y es el sistema que mejor evitaría situaciones claramente injustas y de desigualdad

a día de hoy situaciones claramente injustas situaciones injustas que vienen padeciendo

en los últimos tiempos lo cierto es que hasta ahora la custodia compartida

en muy pocas ocasiones esta es la realidad de los hechos y nosotros creemos que esto debe cambiarse y pedimos por lo tanto el compromiso del propio lehendakari en persona

desde ya mismo y en adelante la custodia compartida como norma preferente gracias

la representatividad y la relevancia de un consejero de administración pública y justicia para responder a sus preguntas y que quiera que le responsa solo y exclusivamente el lehendakari pero en fin me esmeraré en darle satisfacción si usted no se da por satisfecho con la respuesta que le he dado en la primera parte

mayúsculo plantear la cuestión de la custodia compartida desde la perspectiva exclusivamente de los derechos de los progenitores derechos y deberes de los progenitores tal y como usted los formula en su pregunta sí sí lo hace así en su pregunta está así

y afortunadamente la evolución de la jurisprudencia apunta claramente en esa dirección de lo cual personalmente me enorgullezco me satisface porque creo que es una vía correcta a partir de ahí si esta jurisprudencia tiene que incorporarse o no a derecho positivo mire en esta cámara hay

denarekin como le señalaba esta interpelación no busca sino conocer de primera mano cuáles son las iniciativas que su departamento que el departamento

que preside la señora tapia ha llevado en relación con

empresa que actualmente se encuentra en proceso de cierre concursal o de liquidación para ser más exacto

y además lo hicimos expresando rara vez de forma unánime una posición de todos los grupos en la defensa

hablaba de la solidaridad de este parlamento del parlamento vasco con los trabajadores

hablaba a su vez de instar al gobierno vasco y a la diputación foral de álava a que realizara cuantos esfuerzos sean necesarios para garantizar la viabilidad

y señalaba además o instaba nuevamente en el tercer punto al gobierno vasco a que incluyera este nuevo proyecto empresarial en los futuros proyectos estratégicos englobados en el sector de la madera por cuanto ayudaría

ese es el tenor literal de lo que este parlamento aprobó hace como digo prácticamente cinco meses a través de un acuerdo unánime de todos los grupos han transcurrido por tanto cinco meses desde esta toma de posición por parte de esta cámara

con exactitud cuáles son las valoraciones que de todo este proceso hace su departamento y cuáles son las valoraciones sobre aquello que no tiene que ver con este parlamento pero tiene mucho que ver

en relación con lo que tiene que ver con el proceso de liquidación o con la administración concursal

y con eso no décimos que lo sea por la inacción del gobierno vasco que lo sea por la consejera sino porque entendemos que en lo que tiene que ver con la evaluación y con la valoración

y no lo negamos lo compartimos con los trabajadores se están produciendo determinadas distorsiones que creemos pueden dar lugar a un mal resultado para los intereses de los trabajadores y por ende para los intereses de lo que este parlamento manifestó como prioritario que era no solo su solidaridad sino el mantenimiento del proyecto industrial todos somos conscientes de que

por cuanto los jueces suelen tener bastante atención y suelen prestar bastante atención a lo que en ese informe se diga pero no es menos cierto que los gobiernos

nos gustaría que se nos expresara de señalar a la

cuál es la valoración del gobierno cuál es la estimación del gobierno y cuál cree este gobierno que es la posición más solvente o más viable para garantizar

todos señalábamos hace cinco meses que era fundamental para este país por tanto es ahí donde nosotros situamos la interpelación y lo décimos

un primer informe que hizo un primer informe fechado el treinta y uno de julio

las dosis de alarma o de preocupación que he señalado con anterioridad porque en el mismo que únicamente

cuáles son las ofertas recibidas señala que hay tres ofertas pero vemos que en su ponderación y es una opinión subjetiva pero que queremos poner encima de la mesa y que nos gustaría incluso conocer

por este gobierno como decía en la valoración que hace de las tres ofertas recibidas para hacerse con los activos de holtza entendemos que no hay una imparcialidad

por cuanto se emiten o se expresan unos juicios de valor que entendemos pueden condicionar una decisión en este caso el juzgado en contra de los intereses probablemente de los trabajadores y trabajadoras que también era uno de los elementos que este parlamento señaló como fundamentala la hora de mostrar ese apoyo unánime

oferta o en el informe que emite al juzgado el treinta y uno de julio pendiente del que pueda emitir de ahí el sentido de esta interpelación porque somos conscientes de que pueda haber o debe haber otro informe

y por eso les señalamos la preocupación vemos como entorno a una de las ofertas

que es la que está presentada por unabogado lo que hace es recoger literalmente lo que la propia oferta del abogado ha señalado en su encabezamiento y que viene a decir algo así

una empresa global líder de diseño desarrollo y fabricación de todo tipo de materiales constructivos provenientes de la madera con la sostenibilidad como referencia en todos los procesos y productos

convendrá conmigo la señora consejera en que parece acompañarse poco con la realidad

por la oferta de una única persona un abogado no conocemos qué hay detrás

todos somos conscientes de que en el estado español más bien es cierto muchas veces se ha utilizado la figura de abogados para ocultar a los verdaderos interesados en la oferta

creo que es bueno que los trabajadores y que el conjunto de la sociedad conozca de antemano quienes son los interesados en hacerse con los activos y

la viabilidad y porque en cualquier caso al plan de viabilidad al que hace alusión y que ha sido presentado por esta oferta por este abogado nos encontramos con que es el mismo plan de viabilidad

hoja por hoja cambiando únicamente el encabezamiento inicial que ya se había presentado hace año y medio por los anteriores propietarios

por una empresa y que fue rechazado a su vez por las entidades bancarias que tenían que prestar los avales o el prestamo y además vemos

que ese plan de viabilidad estaba fechado hace un año y medio

que un plan de viabilidad hecho para un contexto que se sitúa hace un año y medio probablemente tenga poca viabilidad en un contexto como el actual porque los planes de viabilidad tienen una duración de vida

precisos y que sean exhaustivos y que por tanto ahí no parece que pueda darse

finalizar si el plan de viabilidad de una de las ofertas

gestores si desde nuestro punto de vista y entendemos que eso no tiene por qué ser compartido la parcialidad en el informe de la administrador concursal parece evidente

que se ha interesado y que ha hecho su propio plan de viabilidad y que lo ha tasado y lo ha puesto se contrapone la de un abogado sin conocer qué hay detrás y sin conocer

no estamos ante el riesgo de que aquello que dijo este parlamento que quería poner encima de la mesa que era no solo la solidaridad sino el mantenimiento

de esta empresa por el carácter estratégico se vaya al traste como señalaba hay un elemento que era importante y con esto finalizo se decía

había que tener en cuenta la atención y la opinión de los y las trabajadoras a nosotros nos consta que la opinión de los y las trabajadoras ha sido expresada

los grupos que han estado interesados usted sabrá como nosotros que mientras que una de las partes que quiere acceder

como una parte todavía un poco desconocida en torno a la propiedad o al uso que se vaya a hacer no ha hecho ese mínimo intento y en cualquier caso nosotros lo que le pediríamos aunque desde luego vamos a prestar atención a lo que se nos diga

transmita a la justicia en este caso a la juez las dudas
que este parlamento puede tener y que le tramita también cuál fue el acuerdo plenario porque entendemos que si se trasmite el acuerdo plenario pocas dudas puede tener eskerrik asko matute jauna erantzuteko

bien decía el señor matute estamos en un momento en una administración concursal

el objetivo principal de este gobierno igual que en otros casos es garantizar la viabilidad de esa empresa que esa empresa pueda volver a abrir sus puertas y que se garantice

con un plan de viabilidad en las mejores condiciones posibles ahora bien eso requiere de una actuación muy cuidadosa y de una emisión de opinión como usted conoce y lo ha citado

un breve histórico de qué hemos hecho y dónde estamos el grupo holtza está constituido por tres empresas como usted bien conoce tres sociedades

declarada en concurso de acreedores ya hace un año el diecinueve de octubre del dos mil doce

e instalaciones que ascendían a alrededor de diez millónes de euros y el resto eran existencias

aproximadamente casi trece millónes doce mil novecientos largos

que suponían el cincuenta y tres por ciento del pasivo exigible proveedores

por tanto conociendo estos números se podía prever que era escasa la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores que permitiera reducir los créditos y aplazarlos en unas condiciones que permitieran garantizar viabilidad y por tanto ante una falta de compromisos básicamente por parte de las entidades financieras no pudo ser posible la obtención de nueva financiación

no avienen de alguna forma a garantizar esa viabilidad el veintisiete de diciembre

se aprobó en sede judicial el expediente de extinción de la totalidad de los empleos que afectaban a treinta y nueve trabajadores y previamente el veintitrés de junio fue aprobado otro expediente que afectaba también a treinta y cinco trabajadores es decir setenta y cuatro trabajadores en su totalidad ya en marzo de este año

la administración concursal presenta un plan para realizar todos los bienes y derechos integrados

porque no es otra cosa que un plan de liquidación porque no puede hacer frente a un plan de viabilidad se aprueba en el juzgado el diecinueve de julio del dos mil trece al referirse a un plan de de bienes y derechos se argumenta la imposibilidad de llevar a término la enajenación unitaria del conjunto productivo por no existir en marzo de dos mil trece fecha en la que se ha presentado ese plan de liquidación de una unidad de negocio única

todo el conjunto de elementos materiales en la masa activa quedaba dentro de ese concurso el plan de liquidación proponía presentado por el liquidador concursal en este caso la venta de unidades independientes

la venta a un único comprador de toda la planta completa previa presentación de una única oferta y si ello no fuera posible después acceder a una venta individualizada desde el pasado mes de abril tanto desde el gobierno vasco como de la diputación foral de álava hemos realizados gestiones

de la planta completa esa ha sido la primera actuación del gobierno a pesar de que estábamos en ese proceso judicial qué pretendíamos evidentemente una reactivación

máximo en este sentido se ha implementado se ha llevado a cabo un esfuerzo importante

de las capacidades existentes y de las potencialidades que ofrecen las instalaciones de holtza cuya pérdida en el sector

no lo podemos entender además que pudiera llegarse a esa situación

de segunda o tercera transformación del sector primaria en base a un consumo importante de

hace tiempo ya que se empezó a hacer una declaración a favor de este pino para ser utilizado en multitud de lugares recuerdo que

luego sería realmente algo importante poder llevar a cabo este proyecto empresarial desde el punto de vista tanto del gobierno como de la diputación de álava

todo ello hace que en clave de país y de sostenibilidad los consumos de material que pudieran generarse tendrían un importante efecto tractor en el sector forestar vasco además tanto en la plantación

transporte corte y primera transformación como bien decía usted hasta el veintinueve de julio han sido tres las ofertas que se han presentado al administrador concursal

las ofertas por la adquisición de la planta completa son muy reducidas e insuficientes por tanto no las considera como buenas ha estimado conveniente

a través de una entidad especializada dada la complejidad del sistema

tal como preveía el plan de liquidación aprobado es la sociedad que está gestionando y dirigirá la venta primero tratando de lograr un comprador para esa primera planta completa y en el caso de no lograrlo a través de una subasta

en este momento y de que en caso de que sigan manifestando interés les ha solicitado una nueva oferta económica porque entiende que no se ajusta a la realidad estas ofertas serán sometidas a su estudio y a la posible adjudicación de la planta productiva en base a dos criterios importantes

y en segundo lugar que los parámetros del proyecto industrial que se pretenda desarrollar sean referente a las inversiones a materializar

y es en este punto donde quisiera hacer especial hincapié porque es donde realmente el gobierno y la diputación de álava hemos hecho especial hincapié tanto a la administración concursal como al propio juez lo que le importa a las administraciones en este caso es tener un proyecto industrial importante y que realmente

siendo lo deseable una adjudicación de la planta completa este gobierno como no puede ser de otra manera pondrá además

todos los instrumentos de ayuda actualmente en vigor en el ámbito de la promoción empresarial desde los créditos créditos participativos prestamos avales

como bien dice es realmente importante que el proyecto tenga solvencia económica y en el caso

por un abogado únicamente hubiera sido quizá deseable y estoy de acuerdo con usted en que pudiéramos observar algo más detrás de eso sin embargo contra esa situación es prácticamente imposible hacer nada lo que se ha reseñado desde el gobierno a la administración concursal y al juez

que el gobierno vasco y en este caso la diputación de álava también espera una propuesta y estaría a favor de una propuesta que incorporara los siguientes aspectos como mínimo

posicionamiento de esos promotores en el mercado una capacidad de gestión como empresa de tercera transformación el desarrollo de nuevos

e inversiones garantizando además que esto sea a medio y largo plazo

y un programa de internacionalización que nos permita acudir con garantía después a poner a disposición de esta empresa las nuevas ayudas que vaya a poner el gobierno

por justo el final de lo que ha señalado a nosotros nos alegra oír cuáles son las condiciones que este gobierno

para poder garantizar la viabilidad no ya de la empresa sino del sector

que esas condiciones en absoluto las cumple el abogado y creemos que si esas condiciones que ponemos es decir solvencia económica

la práctica del abogado pantalla es una práctica que por desgracia no se la ha inventado nadie hoy y aquí si no que existe desde hace mucho tiempo y que seguramente usted como yo compartiremos que ha dado lugar a verdaderos escándalos tanto por

de la empresa como por el currículum que puedan arrastrar algunos o algunas y también probablemente haya dado lugar a experiencias que no son así

la falta de claridad nos hace por lo menos ser cautelosos y por tanto ante esa falta de claridad desconocemos la solvencia económica el posicionamiento en el mercado

y es un plan desfasado y rechazado pues también entendemos que no se da caso la capacidad de gestión pues salvo que uno profese una fe incalculable también hay que ponerla muy en cuestión porque no conocemos qué posicionamiento en el mercado y en el sector tiene este abogado con carácter previo otra cosa es lo que venga detrás y en el programa de internalización

con toda la honestidad del mundo porque a nosotros como eh bildu nos da bastante igual cual sea el grupo empresarial que finalmente

al volumen de beneficio que puedan obtener unos u otros lo que nos preocupa fundamentalmente es lo que los trabajadores nos están señalando y los trabajadores tienen una posición clara que tiene que ver

y es una empresa determinada y porque además esa empresa determinada es la única de las empresas que se ha dignado a estar con ellos para ver en qué condiciones podría readmitir

en la perspectiva de incorporar al conjunto mientras que las otras el abogado incluido no ha hecho ningún intento ni ninguna gestión por tanto nosotros reiteramos valoramos lo que se está haciendo no encontramos ahí

pero sí que pedimos a este gobierno que mantenga esa actitud de manera permanente y que además lo haga pública porque entendemos que si esas gestiones

para que no tengamos que lamentar con posterioridad que esas gestiones no llegaron a ser conocidas por todos aquellos que tenían que tener un papel importante en la toma de decisión

en todos estos procesos nosotros creemos que hay que romper pero ese es otro debate hay que romper una dinámica que es la de la no intervención en los procesos de administración concursal sobre todo cuando hay dinero

y que no se ha venido haciendo aquí en este país no sabemos muy bien por qué sería quizás un buen momento para hacerlo y para finalizar señalaba una cuestión

nos ha hablado de cómo se desglosaba la deuda pero yo creo que aunque ahora importe menos y ojalá también es importante decir que esa deuda se debió a una gestión absolutamente inoperante e ineficaz de los gestores anteriores que permitió que teniendo cartera de trabajo que teniendo pedidos que pudieran realizar y que por tanto garantizaba que el sector tenía sentido y que la empresa tenía sentido no pudieron llevarse a cabo porque se encontraron con una deuda que es la que usted ha señalado y ha desglosado que tenía que ver con la mala gestión empresarial y en ningún caso

o con la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de holtza y eso

esta interpelación y es lo que nos motiva a seguir estando vigilantes en toda esta cuestión porque creemos que la posición que están manteniendo los trabajadores es una posición activa y es una posición comprometida no solo con la defensa de unos puestos de trabajo que por desgracia ya han perdido

que en cuestiones más primarias pero que no puede dejarse de lado o que no debe dejarse de lado también lo décimos creemos que incluso hay que estarles agradecidos por la labor incesante que están haciendo para intentar que

desde otro lugar si es necesario o bajo otra marca si es necesario pero manteniendo esa posición de preeminencia

como administración como institución tenemos que guardar un equilibrio y una equidad precisamente las garantías que le pedimos a la administración concursal van en aras a evidentemente garantizar todas estas cosas ya que el propio administrador concursal sea quien solicite o el juez

que presenten todas estas garantías como gobierno no lo podemos hacer si bien estamos en contacto permanente con ambos tanto con el juez como con la administración concursal porque realmente tanto la solvencia económica financiera como la posición en mercados son de futuro de esta empresa y así lo creemos firmemente y en ello vamos a continuar y me va a permitir que más allá de este posicionamiento público que haga hoy vamos a continuar un poco

nuestros técnicos están trabajando mucho y de forma muy continuada y esperemos que den esos frutos tanto con la visión de los trabajadores como con la de los propios técnicos esperemos llegar a bueno puerto pero sí me gustaría hacer referencia a algo que usted comentaba hacia el final y cada vez estamos viéndolo en más ocasiones

a pesar de encontrarse tecnológicamente avanzadas tener equipamiento estar bien posicionadas en el mercado tener personas bien formadas y bien preparadas

y el conjunto de la crisis mundial hace que como consecuencia de todo ello

no precisamente por no tener ni internacionalización ni formación ni tecnología sino por una cierta carencia en gestión y en eso estoy plenamente de acuerdo con usted

una garantía la capacidad de gestión del grupo empresarial que también lo ponemos en nuestras exigencias porque estamos observando que cada vez más es una de las

o una de las principales causas por las cuales las empresas pueden entrar en disolución y nos preocupa porque probablemente y por desgracia esta no será la última crisis que vayamos a vivir y tenemos que estar preparados para la siguiente vamos a continuar siendo exigentes en este sentido y continuar haciendo el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora para